eta herrialdea modernizatzen jarraitzeko inbertitzea hace dos meses celebramos el debate de política general pudimos contrastar nuestra visión del país y valorar la acción del gobierno

a dos mil dieciséis el consejo de gobierno aprobó el anteproyecto de presupuestos el pasado veintisiete de octubre tres días después se registró en este parlamento

en este periodo conscientes de la posición parlamentaria del gobierno y del grupo que lo sustenta hemos trabajado para generar el consenso y el acuerdo necesario que nos permita sacar el presupuesto adelante subrayo la predisposición al diálogo y al acuerdo del partido socialista de euskadi

han contrastado prioridades debatido y consensuado enmiendas para mejorar el proyecto y generar los apoyos suficientes

muestra de responsabilidad compartida lo es también haber consensuado el plan de empleo y reactivación económica la reforma fiscal y el plan de lucha contra el fraude

estabilidad y confianza son activos esenciales para mantener el ritmo de recuperación de euskadi y garantizar las políticas de inversión innovación

e internacionalización orientadas al crecimiento y al empleo hemos conocido años difíciles

años de garantizar las condiciones de euskadi sostener los servicios públicos y atender a las personas sin dejar a nadie atrás ahora los podemos

nos permiten mirar con mayor confianza al futuro estos presupuestos quieren contribuir a dejar la crisis en el pasado y concentrar todos nuestros esfuerzos

esta presentación va a pivotar sobre tres ejes contexto macroeconómico en el que nos encontramos y el contexto económico financiero al que se ha ceñido el gobierno prioridades estratégicas del gobierno para el presupuesto y los objetivos que pretende alcanzar el año dos mil dieciséis

primero contexto macroeconómico y económico financiero la actividad económica mundial está creciendo al tres coma uno por ciento con un comportamiento dispar entre economías avanzadas y países en desarrollo las economías avanzadas

la unión europea mantiene un crecimiento del uno coma nueve por ciento el mejor resultado de los cuatro últimos años la economía vasca ha crecido un tres por ciento

y sitúa la tasa de variación en el valor más alta desde finales de dos mil siete

y los servicios con un tres coma uno por ciento la buena marcha de la economía vasca ha favorecido la creación de empleo neto en el tercer trimestre la variación inter anual del empleo

ha actualizado a la baja las previsiones del producto interior bruto mundial y prevé

los mayores riesgos son la ralentización del crecimiento en china el alza de los tipos de interés en estados unidos y las tensiones geopolíticas en particular la amenaza del terrorismo yihadista en este contexto de incertidumbre mantenemos la previsión de crecimiento del dos coma siete por ciento para este año y para dos mil dieciséis mantenemos el dos coma cinco por ciento estos datos llevan a estimar una creación de empleo del uno coma ocho por ciento este año

poco a poco recuperaremos el empleo perdido los últimos siete años nuestra actitud sigue siendo de prudencia la mantenemos ante la menor o ante la posible menor intensidad del efecto abaratamiento del petróleo

y la necesidad de recuperar la inversión el proyecto de presupuestos que hoy debatimos asciende

la aportación de las diputaciones forales pasa de los ocho mil setecientos treinta y ocho millónes de este año

este volumen supone el ochenta y tres por ciento de los ingresos con los que cuenta el gobierno vasco es necesario destacar que el objetivo

es del cero coma tres por ciento del producto interior bruto esto es cuatro décimas menos que el fijado para el presente ejercicio del cero coma siete por ciento este hecho provoca que la capacidad de endeudamiento neto

inferior en este punto subrayo el valor del concierto económico y el principio de corresponsabilidad fiscal entre las administraciones vascas

y garantía de las políticas públicas en euskadi un principio básico del gobierno vasco es la estabilidad presupuestaria el control del déficit y la sostenibilidad financiera un principio de responsabilidad que seguiremos haciendo compatible con garantizar los servicios esenciales mantener el empleo público evitar la creación de nuevas entidades y sociedades públicas y orientar las inversiones a la promoción del cambio de ciclo económico y la creación de empleo de calidad

prioridades estratégicas del gobierno y objetivos para dos mil dieciséis el marco estratégico del gobierno vasco es acorde con la estrategia europa dos mil veinte

las prioridades del presupuesto para dos mil dieciséis refuerzan la doble misión que fijó el gobierno vasco desde el inicio de la legislatura primero el compromiso con las personas preservar el modelo vasco de cohesión social conformado por los servicios y prestaciones esenciales salud educación y políticas de protección social

apunto nuestras prioridades en este ámbito sistema sanitario que suponga el empoderamiento del paciente sistema educativo equitativo inclusivo

garantía de ayuda social a las personas más desfavorecidas apoyo a las familias y fomento de la natalidad carácter social de la política de vivienda garantía de igualdad efectiva euskera como lengua viva para la convivencia la cultura elemento esencial de desarrollo humano

y al fomento de investigación desarrollo e innovación la apuesta por impulsar el crecimiento implica el esfuerzo inversor incrementamos la cifra de los ejercicios anteriores hasta los mil doscientos catorce millónes de euros

en el ámbito del crecimiento y el empleo las prioridades centrales son impulso a las políticas activas de empleo políticas estructurales de competitividad ciencia e innovación para la especialización inteligente

fomento del emprendimiento impulso a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas política de reactivación financiación del sector productivo cooperación inter empresarial desarrollo del sector primario

turismo y proyección exterior en el ámbito de la sostenibilidad del desarrollo planificación territorial y urbanismo política energética sostenible política de transporte para la mejora de la movilidad impulso del medio ambiente como oportunidad se celebra en parís la cumbre mundial del clima cop veintiuno con la participación e implicación de euskadi

tercero principales características del presupuesto concreto a continuación la plasmación de las prioridades y objetivos generales

isiltasuna mesedez la política de lucha contra la exclusión social está conformada por las prestaciones del sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social en dos mil dieciséis

se mantiene un importe de cuatrocientos noventa y cuatro millónes las ayudas son la renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda con cuatrocientos sesenta y uno millónes

veintidós millónes para cubrir situaciones de vulnerabilidad respecto a la política familiar y desarrollo comunitario la ley de apoyo a las familias establece medidas

sesenta y tres millónes de euros entre ellas destacan las ayudas de apoyo a las familias con hijos e hijas así como las ayudas para la conciliación de vida familiar y laboral esta estrategia es una prioridad del gobierno comprometida en el debate de política general

demografía natalidad y familia suponen un reto de futuro global que debemos abordar en euskadi desde una visión estratégica e integral

las políticas activas de empleo tendrán una dotación presupuestaria de trescientos treinta y ocho millónes de euros de los que ciento once serán para formación profesional no reglada

con casi doscientos millónes de euros para conseguir la activación laboral del máximo número de personas en el empleo estable y de calidad en este ámbito tal y como comprometimos incrementamos un cincuenta por ciento la dotación para el programa lehen aukera

la primera experiencia laboral entre la juventud vivienda la política de vivienda

visesa con ciento treinta millónes de euros alokabide con cincuenta y siete millónes y orubide con cinco millónes y también por el propio departamento

el objetivo consiste en incrementar la presencia del parque de alquiler como fórmula de resolución de necesidades favoreciendo no solamente la nueva edificación sino la rehabilitación

y la ayuda directa al pago del alquiler justicia destinamos ciento cuarenta millónes de euros para continuar la modernización de la administración de justicia

fiscalías y al instituto de medicina legal de los mejores medios materiales tecnológicos y personales además se destinan treinta y cuatro millónes

y a articular medios alternativos a la resolución judicial de los conflictos destaca la atención a menores la asunción de los puntos de encuentro familiar y la asistencia jurídica gratuita investigación científica

el gobierno aprobó en dos mil catorce el plan de ciencia tecnología e innovación dos mil veinte desplegando una política basada en la especialización inteligente

que conjuga las capacidades científico tecnológicas con las empresariales es una prioridad para el gobierno porque constituye una palanca fundamental para transformar

contará con trescientos quince millónes de inversión además de los gastos de personal del sistema educativo y del sanitario destinados a la investigación

desempeña el papel de impulso de la estrategia de especialización inteligente el programa de investigación científica cuenta con un presupuesto de treinta y cuatro millónes permite incrementar la dotación a los centros de investigación básica de excelencia

se añade el contrato programa de investigación con las tres universidades vascas que asciende a treinta y cuatro millónes el programa de investigación y desarrollo agropesquero cuenta con una dotación de dieciocho millónes de euros que además se consolidan los programa de innovación sanitaria como biocruces biodonostia bioaraba o bioef así como de administración e innovación pública

con una dotación de cincuenta y uno millónes para la financiación de los centros de investigación el programa emaitek y la agencia vasca de innovación innobasque

el gasto en la política de agricultura ganadería y pesca alcanzan los ciento doce millónes de euros de los cuales sesenta y uno corresponden a los fondos europeos

el programa agricultura y desarrollo rural y litoral dispondrá de setenta y ocho millónes que incluyen la gestión de cincuenta y uno millónes de fondos agrarios europeos y en materia de pesca el gasto ascenderá a catorce millónes y la principal dotación está destinada a la mejora de las estructuras comerciales y pesqueras

suman un importe global de ciento diez millónes de euros

con ochenta y uno millónes innovación y estrategia de competitividad con nueve millónes estrategia de estructura y apoyo con dieciocho millónes y seguridad industrial

la política energética se desarrolla a través del ente vasco de la energía y cuenta con un presupuesto de treinta y cinco millónes de euros legegintzaldi honetan

tras una crisis profunda y prolongada iniciada en dos mil ocho transitamos

y la creación de empleo la previsión de crecimiento para este año el dos coma siete por ciento casi duplica el crecimiento del pasado dos mil catorce

ha revertido la tendencia de destrucción de puestos de trabajo y aunque en términos moderados la economía ha vuelto a generar empleo hace un año teníamos ciento sesenta y ocho mil setecientos veintinueve personas inscritas en lanbide hoy son

un diez por ciento menos este es nuestro empeño y lo estamos logrando

afiliadas a la seguridad social somos prudentes y también muy conscientes del momento de oportunidad para la consolidación de la recuperación mantenemos los objetivos aprobados en septiembre del dos mil trece treinta y dos mil empleos incentivados

setenta y cinco nuevos proyectos estratégicos de investigación concluyo afrontamos este debate con el objetivo de ensanchar la vía del entendimiento presupuestario y económico institucional y político este es el camino colaboración institucional y concertación público privada

he trabajado para favorecer una prima de acuerdo y colaboración entre instituciones y partidos políticos sigo creyendo en ello el ejercicio dos mil dieciséis es fundamental para euskadi si se mantiene la tendencia será un año de recuperación económica y empleo un año para asentar las bases del futuro de euskadi

futuro social y futuro político en dos mil trece el gobierno tuvo que hacer frente a reducción de capacidad presupuestaria de mil cien millónes de euros y gestionar

tuvimos que aplicar el rigor en dos mil catorce y dos mil quince

el proyecto de presupuestos que debatimos supera

todos los departamentos cuentan con más recursos pero vamos a mantener el rigor y la consolidación fiscal garantizar la solidaridad y los servicios públicos

y crear las condiciones que garanticen el futuro consolidar el crecimiento y la creación de empleo tenemos un cometido compartido por todos los grupos reitero mi compromiso por el acuerdo y la colaboración en el ámbito económico

destaco ante este parlamento y ante la sociedad vasca ese esfuerzo de responsabilidad y garantía de estabilidad

la necesitamos para seguir creciendo crear empleo de calidad y afrontar

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari muchas gracias por leernos

ya las conocíamos y

un dato y no me voy a perder en muchos más este presupuesto para el año dos mil dieciséis respecto al del año dos mil quince

en que tiene casi trescientos millónes de euros más que parece que son pocos pero que traducido en pesetas de las antiguas son cincuenta mil millónes de pesetas que se dice pronto

pero es mucho dinero estos trescientos millónes de euros y estos trescientos millónes de euros en que se incrementa este presupuesto van directamente al pago de la deuda

incluido el incremento del uno por ciento y se acabó se acabó y no voy a entrar en fin

estamos por ver que bajan algún año señor consejero algún año veremos de momento solo hemos visto que han subido de año en año incluso se duplicaban cuando el paro era cero el paro técnico del cinco por ciento

qué presupuesto nos ha traído hoy el lehendakari y el gobierno vasco nos ha traído el mismo presupuesto del año pasado nos dice que su prioridad es el empleo y uno se sorprende porque de esos trescientos millónes de euros al empleo o a la inversión

y yo creo que deberíamos de volver al debate inicial del primer debate de presupuestos al inicio de esta legislatura cuando alguno se pensaba en que la crisis era una cosa pasajera

y que íbamos a tener los ingresos de antes y que las cosas iban a funcionar como antes y nosotros le pedimos a este gobierno que se adecuara a la realidad

que esta crisis que empezó la legislatura pasada y ha continuado en esta

quién tiene dinero y quién no tiene quién tiene que pedir prestado quién lo puede devolver y quién no lo puede devolver

al igual que el anterior del partido socialista no ha hecho los deberes no nos ha adecuado el gasto corriente a la nueva realidad

seguimos con un presupuesto inferior al de hace cuatro o cinco años

reales fiscales pese a subir los impuestos a todos los ciudadanos hace ya más de dos años que se subieron los impuestos

en este presupuesto no se van a crear nuevos entes sociedades fundaciones oiga usted va a terminar la legislatura con más de los que empezó con más de los que empezó

así de claro tampoco en eso hemos ahorrado nada absolutamente nada ni hemos cambiado la estructura del presupuesto hemos consolidado el gasto

y cómo se paga eso a costa de qué se paga pues se paga a costa

de lo fácil de disminuir

de determinadas personas de este país y de como decía el consejero de hacienda inejecutar o presupuestar menos las inversiones y las partidas destinadas al empleo que es lo que ocurre en este presupuesto de esos trescientos millónes de euros cuántos van a la inversión ninguno y después del acuerdo con el partido socialista qué ocurre con la inversión que baja respecto al año anterior por qué pues porque más de veinte millónes de las enmiendas del partido socialista son para gasto corriente capítulo segundo y cuarto a costa de qué

la cuenta es muy fácil menos veinte millónes en inversión ese es el acuerdo en esta materia cuando hablamos de creación de empleo o el apoyo al empleo

me parece muy bien que usted esté muy contento de que tenga este acuerdo porque es lógico usted va a sacar estos presupuestos los va a aprobar no nos aportan nada usted decía el año que viene puede ser un año muy bueno y va a ser muy bueno y esperemos que sea muy bueno pero no será porque este presupuesto aporte algo

nada ninguna medida ninguna novedad la prioridad es el empleo

pues no la vemos en ninguna no la vemos en ninguna no vemos que se incremente eso en absolutamente nada se mantienen entes

absolutamente inútiles para los vascos se mantienen gastos por ahí por ahí sí

sabemos para qué sirven para tener dos sueldos oficina etcétera

y es que aquellos señores tampoco lo quitaron que oportunidad tuvieron de hacerlo cuando estaban en el gobierno oportunidad tuvieron de hacerlo cuando estaban en el gobierno tampoco lo hicieron

se incrementa la deuda ustedes se quejaban mucho de la deuda de aquellos señores del gobierno del partido socialista pero ustedes la van a dejar mucho más elevada

y eso han sido ustedes hombre en colaboración con aquellos señores que

hace cuatro años le criticaban al señor lópez mucho por emisión de deuda pues ustedes no han parado no han parado ningún mes todos los meses

la inversión de este gobierno prácticamente es nula

la señora consejera y este gobierno que se han pasado cuatro años exigiendo

que por cierto se han hecho en ninguna legislatura dos mil quinientos millónes de euros en la y el gobierno de españa en la peor situación del gobierno de españa

qué ha hecho con las líneas tres cuatro y cinco del metro congelarlas porque es que no tenemos dinero qué ha hecho con los tranvías

qué han hecho con los tranvías que iba a haber dónde están

cero a la hora de exigir a los demás son muy rápidos a la hora de cumplir sus obligaciones son tan lentos tan lentos que seguimos esperando que algún día se cumplan

eso sí mantenemos los impuestos más altos ahora que está de moda esto del concierto económico

y algunas comparativas que se hacen y llevamos varios días oyéndole

y explicar cómo madrid nos gana en competitividad fiscal por ejemplo porque se pagan mucho menos impuestos en madrid que aquí

y ya que hablamos del concierto económico y los fueros y la famosa nación foral habría que recordar que en fin que uno de los conceptos básico era la exención de impuestos era que los vascos no pagábamos impuestos y resulta que aquí

nos estamos convirtiendo en lo contrario pagamos más impuestos que nadie y nuestras empresas pagan más impuestos que nadie

para qué para mantener la estructura del gasto corriente para mantener fundaciones hemos pasado en su día este gobierno los anteriores del partido nacionalista vasco

a crear organismos autónomos entes como ya empezó a ser aquello tal ahora estamos en la época de las fundaciones ahora hacemos fundaciones cada año

y al final es lo mismo porque cuestan lo mismo nos cuestan lo mismo y le repito para mantener esta estructura de gasto que a la inversión

usted nos hablaba del crecimiento económico que tenemos que vamos a estar cerca del tres por ciento y yo le reconozco y le creo a su consejero de hacienda cuando decía que básicamente eso era por el crecimiento de la demanda interna y es verdad de la demanda interna es decir de las familias y de las empresas y este gobierno está ayudando a eso o está haciendo lo contrario

que las familias o las empresas puedan gastar más y tirar de la economía sino todo lo contrario eso es lo que está haciendo este gobierno

es las ayudas a las familias y a la conciliación de la vida familiar y laboral

esas ayudas se recortan el siete por ciento como el anterior y como el anterior y además ustedes se han negado a que tengan el carácter de ampliable

o a que sean un derecho subjetivo con aquellos señores también es verdad es decir

en las ayudas a las familias con hijos se rebajan las ayudas un siete por ciento claro se rebajan un siete por ciento

y que no sean ampliables oiga son sus presupuestos es lo que viene

lo que parece un poco paradójico es que el lehendakari nos venga a decir que esta es la prioridad si fuera la prioridad hubieran quitado la rebaja del siete por ciento o incluso la hubieran incrementado o la hubieran hecho ampliable y no hasta que se gaste el dinero como hasta ahora que nunca llega que nunca llega

por comentar el presupuesto que ustedes nos han traído si esta fuera otra de las prioridades del gobierno real digo se incrementaría esa partida por lo menos para acercarse a la del dos mil doce

del dos mil doce en treinta y siete millónes de euros frente a sesenta y cinco millónes de euros que había presupuestados en el dos mil doce otra cosa es que luego se gastarán o no que aquí también sabemos que el papel lo aguanta todo

y luego se inejecutan en palabras del consejero de hacienda porque es que hay que hacer ahorros y siempre es en los mismos sitios

ahora y en el futuro y que quiere que le diga de lanbide cada año nos cuesta más

que es la intermediación laboral es prácticamente nula

sus palabras de no hace tanto tiempo es que las empresas pasan de lanbide

lo que demuestra es que tenemos una estructura una superestructura que su principal función que es

que la gente encuentre trabajo y pueda trabajar no se cumple

por lo menos yo entiendo que hasta al señor consejero le gustaría que lo hiciera pero la realidad es la que es

que sufren la inejecución no solo en lanbide sino también en otros departamentos

a mí me hace mucha gracia es decir no me hace ninguna gracia

el gobierno del pp es el que recorta el pp recorta y los demás son aquí fantásticos

y uno coge y dice y qué recorte habrán evitado y

somos el gobierno que no va a devolver la extra de navidad han evitado ustedes unos recortes fantásticos y dice y esta bajada del siete por ciento en la rgi han evitado este recorte los socialistas pues tampoco lo han evitado lo mantienen

en las ayudas a las familias con hijos el recorte ese lo han evitado

y la bajada del siete por ciento a la conciliación de la vida familiar y laboral se ha rebajado tampoco

se mantiene y entonces uno se pregunta

señores del partido socialista tan sociales con tanta sensibilidad social tan en contra de los recortes

bueno no perdón sí claro tuvieron la mala suerte de tener que recortar cuando gobernaban en españa las pensiones los sueldos de los funcionarios cuando gobernaban aquí todas estas medidas pero cogen y las mantienen y las mantienen y ahora se las mantienen además al partido nacionalista vasco y uno se pregunta

alguien que está tan a favor de los funcionarios de las familias de la conciliación cómo puede hacer esto por qué será porque evitan los recortes sociales

y yo yo no sé si van a tener el valor de salir a defender el presupuesto

quedarse en explicación de voto porque no hay defensa pero va a tener su gracia oírles hablar de cómo

este presupuesto no produce recortes sociales o en su caso cómo el derecho a la vivienda

que es lo que viene en este presupuesto ese tan cacareado derecho a la vivienda que íbamos a tener todos los vascos y que según este gobierno decía que eso

no va a ser doscientos cincuenta euros exactamente igual que el año pasado pero antes se llamaba complemento de vivienda y ahora se va a llamar derecho subjetivo de vivienda

sí la hay sí la hay nosotros la hemos planteado nosotros la hemos planteado nosotros hemos dicho donde estimamos que se puede recortar

dónde queremos que efectivamente se invierta para poder crear empleo y ayudar a crear empleo y lo hemos hecho con más de doscientos y más de seiscientos enmiendas nosotros sí subimos las partidas

o las inversiones que también crean empleo en hospitales y escuelas más de veinticinco millónes y además

a la fp a los centros concertados al trilingüismo a las becas se pueden incrementar las becas en más de diez millónes de euros todo eso se puede hacer se pueden suprimir los recortes sociales se pueden incluso hay partidos en esta cámara que cada

nos traen una iniciativa para que el gobierno vasco aporte las cantidades necesarias para que las ayudas de emergencia social

estas proposiciones cada tres meses claro el gobierno vasco la deja como estaba es decir

va a seguir sin llegar se acabará en el mes de mayo y

pero viendo las prioridades de las enmiendas del partido socialista descubre harto perplejo

y digo con harto perplejo porque si esta hubiera sido la prioridad del partido socialista en este acuerdo

así igual se cubría la cantidad necesaria pero es evidente que tampoco esta era la prioridad del partido socialista

con lo cual la pregunta que nos tenemos que hacer es este presupuesto y este acuerdo en qué beneficia a los ciudadanos a los vascos en general estos más de cincuenta mil millónes

qué les va salvo la subida del uno por ciento de los funcionarios que evidentemente a ellos sí les va

al resto de los ciudadanos en qué van a verse mejorados pues nosotros no encontramos que vayan a mejorar en absolutamente nada

en este mismo parlamento verdad de otra iniciativa del partido solidario por excelencia

en el pacto presupuestario que hicieron oye pues este año se les ha vuelto a olvidar tampoco ha sido se queda como estaba

no han incrementado ni en un euro las ayudas a la cooperación que evidentemente son muy inferiores a las que había hace años

pues mire si todos estamos de acuerdo en eso podríamos incrementarla permítanme

que esa sea la voluntad o la capacidad de llegar a ese acuerdo yo estoy de acuerdo con el lehendakari en una cosa estamos creciendo y estamos creando empleo

no porque este gobierno en estos cuatro años haya

que sea reseñable porque seguimos con los mismos presupuestos con los mismos presupuestos con la variación de

de aquellos señores los mismos las mismas medidas las mismas todos los programas y todos los planes que hay

en estos cuatro años ni una sola medida nueva nada

españa crece y las medidas que se han tomado en españa

se crea empleo y aquí se crea empleo pero vamos a remolque crecemos menos no solo este año y el anterior y el anterior

por qué el país vasco no está a la vanguardia del crecimiento de españa que era donde teníamos que estar

por qué no estamos nosotros tirando del carro y sin embargo vamos agarrados al carro

vamos viviendo de lo que hacen los demás nosotros no hemos tomado ninguna medida cuál era el programa de inicio de esta legislatura porque españa tiene un problema demográfico pero es que el nuestro es el doble

que teníamos el problema de que somos los mismos que hace treinta y cinco años pero treinta y cinco años más viejos y hoy pues

somos los mismos eso sí somos más ricos porque como

el país vasco es más rico como repartimos entre los mismos

pero esa es una riqueza ficticia y falsa porque una sociedad que no crece por debajo que es por donde tiene que crecer

a vivir de la subsistencia de otros y cuando hablamos de las pensiones claro no se trata en este momento de reabrir ese debate pero claro no se puede

ser más deficitario más deficitario más deficitario oiga y hasta cuándo y vamos a adoptar alguna vez alguna medida para que esto cambie

y ya que aquellos señores tragaban con todo podían haber puesto alguna medida que tire

no hay nada por eso le digo que yo estoy de acuerdo con el señor lehendakari en que el año que viene puede ser muy bueno

pero puede ser muy bueno dependerá del resultado del veinte de diciembre claro sí claro

porque seguiremos creciendo y seguiremos creando empleo y adoptando las medidas que hay que adoptar para que ese empleo sea de mejor calidad cada vez

a las políticas que nos llevaron al dos mil doce por cierto avaladas por ustedes

los siete presupuestos del señor rodríguez zapatero los aprobó el partido nacionalista vasco como unos campeones

de sus presupuestos y eso nos llevó al dos mil doce

cuando lo que se está planteando es que hay que volver a aquello pues ya veremos el dos mil dieciséis puede ser un año muy bueno o puede ser un año tan malo como el dos mil doce pero claro la prima de riesgo hoy

en aquellas fechas estaban en seiscientos cincuenta o más eso ocurre

en el que gobierna se lo va a devolver y hay quien tiene credibilidad y quien no la tiene

por eso le digo que hombre el año dos mil dieciséis puede ser muy bueno sí para todos el mundo para todos los españoles incluidos los vascos

puede ser muy malo pero yo en el caso de este presupuesto señor lehendakari creo

se ha perdido la legislatura que se empezó a perder ya con aquellos señores que tampoco se atrevieron a hacer lo que había que hacer que era modificar la estructura del gasto del gobierno y seguimos con los presupuestos fíjese

yo no sé para qué lo hacen porque prorrogan el que tienen se quedan con los trescientos millónes de euros más

el del dos mil quince incrementan trescientos millónes que van al pago de la deuda

este es un presupuesto que apuesta por la creación de empleo por el crecimiento económico nosotros con perdón no lo vemos y como no lo vemos pues evidentemente
vamos a pedir la devolución del presupuesto al gobierno muchas gracias eskerrik asko

babestu izan duzunean esaten duzu claro que crecemos crecemos porque crece españa

desequilibrados de la unión europea en paro y deuda solo por detrás de chipre

entre los veintiocho españa suspende siete de los catorce indicadores que analiza la comisión europea

actualice los presupuestos para cumplir con el déficit el ejecutivo comunitario avaló el presupuesto del dos mil dieciséis con la condición

el déficit y se estima que tendrán que hacer unos ajustes en las cuentas

es decir el partido popular presenta y ha aprobado unos presupuestos que son papel mojado ese es el rigor esos son los datos de españa

habla de partidas sociales y ayudas sociales que podremos analizar después los niveles de pobreza de españa siguen estando entre los más

esa es su realidad usted dice que no hay nada nuevo por eso le invito a que nos aclare por qué cuando antes no ha presentado usted nunca una enmienda a la totalidad el partido popular ahora sí lo hace

empieza una campaña electoral preguntaba en qué iba a beneficiar

es de doscientos noventa y cuatro millónes y ciento ochenta y uno van a ir a pagar la deuda según el calendario de amortización establecido por cierto una deuda

apoyo con el apoyo del partido popular y aquello hay que pagar

sesenta millónes van a ir a retribuciones para los empleados públicos insiste tanto en ese dato que no sé si es que ustedes están en contra de ello tal vez sería bueno que lo aclararan pero desde luego nosotros consideramos que ya es hora de que vaya recuperando lo que han ido perdiendo durante muchos años

poco a poco vayan recuperando trece coma siete millónes para innovación usted que tanto dice que

apuesta trece coma siete millónes para la innovación le parece a usted poco porque además estaba aquí diciendo y alardeando de que innovación no se está haciendo

no sé si lo puede ver espero que se fíe de lo que yo voy a leerle bueno pues la primera columna es el país vasco en más i los primeros los que más invertimos sobre el producto interior bruto y por aquí atrás están ustedes castilla la mancha galicia castilla león en amarillo cómo puede decir que no se

cuando con diferencia aquí es donde más se invierte dice que no invertimos en cooperación

cuatro millónes más para ayuda a refugiados siete millónes más para desde luego ayudar a las personas apoyando la cartera de servicios sociales dice usted que no van a tener repercusión en la vida de las vascas y de los vascos

un uno coma cinco por ciento de incremento en el departamento de educación a eso se destina el incremento de este presupuesto esa es la realidad

ha empezado a decir empleo y dice dónde está el empleo lehendakariak

financiación pymes y autónomos catorce coma uno fomento del emprendimiento veinticuatro millónes fomento del empleo juvenil veintitrés coma cinco millónes empleo y formación ciento treinta y tres coma uno millónes la apuesta es clara la apuesta es coherente la apuesta es interanual y los resultados se van viendo

sería un error hacer una valoración eufórica de los datos que ayer pudimos conocer hay que analizarlos y actuar frente a ellos con prudencia y seguir trabajando por la línea emprendida

de acuerdo con nosotros señor damborenea que los datos confirman que algo está cambiando y algo está cambiando para bien y que las medidas que se están adoptando

se esté dando usted hablaba del gasto corriente y

diciendo que no se adecúa a la realidad en primer lugar es importante decir que el gasto corriente no siempre tiene una connotación peyorativa

que la inversión no siempre tiene una connotación positiva no siempre la inversión estará bien si aquello en lo que se invierte es necesario para la sociedad vasca y el gasto corriente estará mal

no vale para la sociedad vasca pero y mantener un quirófano en buen estado porque eso es gasto corriente

de los centros educativos porque eso es gasto corriente y el combustible de los coches de la ertzaintza porque eso es gasto corriente quiere saber exactamente cuánto del capítulo segundo va dirigido a gastos de sanidad

del gasto corriente del gobierno vasco quiere saber usted cuánto del gasto corriente del gobierno vasco va dirigido a educación el cuatro coma cinco por ciento esa es la realidad ese es el gasto corriente un gasto corriente que este gobierno vasco se niega a recortar si eso supone recortar calefacciones en centros educativos si eso supone

del mantenimiento de nuestros centros hospitalarios ese es un gasto corriente absolutamente necesario

a costa de recortar derechos hombre señor damborenea es que nos cuesta mucho que el partido popular venga a hablarnos de

ustedes que han liderado una ofensiva para recortar derechos una ofensiva para recortar derechos para dejar fuera del sistema de ayudas

ustedes que apoyaron en el dos mil doce junto con el partido socialista que estaba gobernando entonces a ese recorte del siete por ciento para acceder a las ayudas

por qué lo pusieron es la pregunta cómo puede el partido popular

recortes gastos ineficaces evidentemente usted representa un proyecto político que en absoluto que en nada tiene que ver con el proyecto político de este gobierno cuando usted se está refiriendo a

los destinados a e i te be los destinados a las delegaciones del gobierno de las delegaciones vascas en el extranjero

que nosotros consideramos que son absolutamente necesarias y más en los tiempos de crisis económica actuales porque realmente son fundamentales para la estrategia basque country conocen el país donde están perfectamente

que ofrecen a las empresas que pretenden llegar a esos sí es así señor damborenea

en los lugares y en los países donde están las delegaciones

para ayudar a las empresas y los distintos agentes que quieren llegar a esos entornos

se empeñan mucho en decir aquellos señores gobernaban aquellos señores gobernaban pero es que aquellos señores gobernaban con su apoyo

ustedes son corresponsables de ellos porque supongo que no solo sería cuestión de coger la presidencia en el parlamento algo más hablarían alguna capacidad más tendrían de intervenir en las decisiones del gobierno no se libren ahora de la responsabilidad de todo aquello no no es razonable uno tiene que asumir las responsabilidades de sus actos no siempre serán acertadas las decisiones no siempre serán pero tiene uno que asumir porque lo contrario es un ejercicio de irresponsabilidad política

otra vez a la deuda y que íbamos a dejar la deuda más alta

comparar datos de deuda la deuda de las comunidades autónomas en el dos mil catorce

sabe cuál era la deuda de castilla la mancha en el dos mil catorce treinta y cuatro coma cinco no señor damborenea es que ustedes gestionan tan bien y nosotros recordamos a cada uno

cómo predica con el ejemplo allí donde toma decisiones de gobierno porque es muy fácil hablar es muy fácil hacer un discurso político pero luego hay que ir a los hechos y ver lo que cada uno hace castilla la mancha treinta y cuatro coma cinco por ciento por cierto dos puntos más que cataluña

pero castilla la mancha dos puntos más islas baleares veintinueve coma cinco por ciento murcia veinticinco coma seis por ciento sabe cuál es el nivel de deuda del país vasco catorce coma diez por ciento veinte puntos menos que castilla la

y además es importante que usted sepa que el incremento de deuda que ha habido durante esta legislatura cumple escrupulosamente de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera la inversión es nula

es otra de las afirmaciones que usted hace la inversión los créditos de pago de los capítulos inversores de este presupuesto sexto

suponen un montante de mil doscientos trece millónes de euros frente a los

anterior medio ambiente y política territorial quinientos cuarenta y cuatro coma nueve millónes educación política lingüística y cultura ciento cinco coma cinco millónes desarrollo económico de competitividad doscientos sesenta y tres coma tres millónes por ponerle solo unos

inversión importante pero es la única la única inversión que es gobierno de españa está haciendo aquí una inversión que estaba prevista para que se terminara hace

y que se está demorando la única inversión y hablaba usted de la señora consejera bien la señora consejera

con todo lujo de detalles las inversiones que se están

en euskadi y se lo vuelvo a leer por si tiene alguna duda les dijo metroaren hirugarren linea artxandako tunela

nosotros utilizamos y practicamos el método insistencialista nos será por nuestro empeño

ofrecerles textos para ver si los ven porque se lo han dicho bien claro pero da igual porque insisto no hay más sordo que el que no quiere oír

mantenemos los impuestos más altos y

no disponemos de ese dinero a mí me gustaría saber

ha manejado a la hora de hacer esta afirmación es decir antes de hacer eso ustedes habrán hecho un análisis de datos para decir en euskadi tienen los impuestos más altos

el dinero que se revierte en la sociedad es menor porque usted qué ha valorado

es el cuarenta por ciento del total de todo el estado usted ha valorado que en euskadi en salud

el cincuenta por ciento más que en andalucía usted ha valorado que el setenta y cinco coma dos por ciento

que va a educación y salud universal y protección social para todas las personas que tienen grandes o problemas económicos setenta y cinco coma dos por ciento

ha dicho que efectivamente euskadi es pionero en cuestiones

sociales esa es la verdad sabe cuánto se invierte

en renta de garantía de ingresos setenta veces más que en castilla la mancha setenta veces más la media de españa es en concreto de once coma cuatro euros por habitante y en euskadi ciento sesenta y tres euros por habitante

que aquí disponemos de menos dinero cómo se puede decir eso de ciento sesenta y tres a once coma cuatro euros nosotros el cero coma siete por ciento para rgi

cuánto destinan galicia madrid comunidad valenciana o castilla león cero coma siete cero coma uno cero coma dos y cero coma uno esa es la realidad

es la realidad y no otra y en cuanto a calidad también le podemos dar indicadores porque no solo hay que ver cuánto se invierte hay que ver cómo mejora

de esa sociedad en la que está invirtiendo y podemos ir a analizar

educación en euskadi somos líder en excelencia educativa

de profesionales por la ética un informe de profesionales independientes que valora las políticas educativas en el estado y sabe qué datos da dice es excelencia

tasa de abandono escolar temprano sabe cuál es la tasa de abandono en euskadi siete coma dos y en españa hogeita bat koma bederatzi de zazpi koma bi a hogeita bat koma bederatzi usted cree que eso es casualidad

eso es porque aquí se invierte en unas políticas determinadas que van dirigidas a garantizar el futuro de este país que empieza por la formación y por la educación otro dato

en españa sesenta y cinco coma ocho otro dato población con nivel de educación superior cuarenta y ocho coma nueve en españa

se invierte en todos los niveles formativos y le doy también datos de la mejora de la salud

al nacer en euskadi es casi tres años superior que la media europea de la ue usted que la tasa de mortalidad infantil en euskadi se sitúa en un dos coma siete por

niños nacidos vivos comparando con un cuatro coma uno de la media europea y todo eso sabe usted y sabe usted cómo valora

como buena o muy buena y todos estos dan porque tenemos un sistema sanitario bueno por el que se apuesta y en el que se invierte ahí está el dinero

ahí está ayudas

a la conciliación y a las ayudas de emergencia social

emergencia social en el presupuesto del dos mil doce eran de diecisiete millónes y actualmente son de veintidós millónes y si algunas enmiendas de las que se van a aprobar se aprueban

seis millónes de incremento un incremento considerable nada en absoluto desdeñable las ayudas a la conciliación han subido también de forma importante y no hay ningún problema este año para poder atender a todas las peticiones que se están recogiendo

decía que el gobierno se niega a hacer el gobierno lo que hace es priorizar la consideración priorizar lo que debe priorizar

ampliable de lo que son los derechos subjetivos eso es lo que tiene que hacer

se refería también a que se consolida la estructura que existe y que se mantiene en

entes que podrían desaparecer o que podrían reducirse considerablemente le vuelvo a decir a usted estas existían

fusionar por fusionar no es la forma más inteligente de recortar el gasto social en absoluto contribuye a nada responder

en esta cuestión todas esas sociedades a las que usted ha hecho referencia pueden tener ámbitos de cooperación y colaboración pero eso no quiere decir

porque dejarían de dedicarse a la especificidad y a la especialización con la que ahora

con la que ahora hacen su trabajo usted en su enmienda dice que estos presupuestos no apuestan por el país

exactamente en la enmienda a la totalidad y desde luego no estamos en absoluto de acuerdo con ustedes apuesta por este país porque es

un planteamiento un presupuesto humano hecho con un enfoque humanista que tiene y garantiza como hemos dicho antes y salud universal para todas las vascas y todos los vascos y un modelo potente de protección social para aquellas personas que están en una situación más vulnerable

porque apuesta por la educación porque apuesta por el desarrollo inteligente porque apuesta por la innovación porque apuesta por la generación de empleo porque apuesta por la reactivación económica para que en este país se genera riqueza para todas para todas las empresas y así podamos ir saliendo del contexto y de la situación de crisis en la que estamos y apuesta por el futuro de este país

pretendiendo atender a las necesidades que son infinitas

que generaciones futuras tendrán eso sería no apostar por este país por el futuro del país

y tiene presente y tiene que tener futuro y las generaciones futuras tienen que tener garantizado un gobierno responsable tiene que presentar un presupuesto

que garantiza la respuesta a las necesidades actuales que establece claramente cuáles son sus prioridades sin hipotecar la respuesta a las necesidades que un futuro surgirán

esta última frase suya señora gorospe me ha recordado a un concejal

de mi partido en un pueblo de bizkaia que preguntándole y por qué vas a votar del presupuesto me decía es que está cuadrado es que cuadra los ingresos y los gastos bueno pues

de este presupuesto me ha recordado no sé por qué me ha recordado esa frase pregunta usted por qué hacemos enmienda a la totalidad

yo voy a hacerle memoria de esta legislatura y lo que nosotros como grupo popular hemos hecho primer presupuesto del gobierno

oiga nos quedamos con la palabra en la boca se retiró el presupuesto

y ni siquiera nos avisó que se retiraba el presupuesto vale bien bueno de acuerdo

siguiente presupuesto no queremos acordar con más de uno tal tenemos un acuerdo con el psoe pero estamos oiga nos aceptaron cuatro enmiendas y se montó un pollo en la comisión no sé si usted la recuerda no está el que lo montó ahora en este instante verdad pero un pollo vamos que quedó claro para todo el que quisiera entenderlo que esto

de apoyar o mejorar o hacer algo oiga cuatro enmiendas el año pasado

y ayudar terminamos votando en contra del presupuesto el año pasado digo para que usted lo recuerde

es que no se pudo negociar nada y este año según han anunciado

quedó bien claro y patente que no se aceptaban enmiendas de nadie más

pues ya de entrada le presentamos la enmienda pidiendo la devolución por qué vamos a andar con bobadas no o tenemos que disimular

nosotros no estamos aquí para disimular nos quedó claro desde el principio

que no se va aceptar ninguna enmienda entonces podemos hacer aquí el paripé de que estamos aquí todos no va a ningún sitio ya está cerrado el acuerdo

nosotros no le hemos votado a este gobierno a favor ningún presupuesto se lo recuerdo

pues le recuerdo que aquellos señores les dejamos de apoyar por eso por eso

porque nuestro acuerdo cuando nos dice el acuerdo con el partido socialista nosotros lo hicimos por escrito y público eso es lo que acordamos

por escrito y público cosa que de este acuerdo que menos presupuestarios de todo

ni público nosotros acordamos con aquellos señores por escrito y público cuál era el compromiso nuestro y para qué apoyábamos aquel gobierno nosotros no hemos engañado nunca a nadie me dice usted que españa es de los países con más desigualdades del euro pues claro

y usted me dice ahora claro las cosas están cambiando claro que están cambiando después de cuatro años de mariano rajoy y del partido popular claro que están cambiando

si es que parece que les parece bien aquello claro pues claro y encima me hace la comparativa con castilla la mancha oiga castilla la mancha

solo ha gobernado la legislatura pasada de todas las demás y se encontró

el doble de la que tienen hoy tenían el doble fíjese en los datos

castilla la mancha claro tenía el doble de lo que tiene hoy y

y vamos a ver cómo acaba que esa es la siguiente

vayan recuperando los recortes que le ha hecho quién el pp el

que fue el de la paga extra ya los devuelve y este gobierno y el partido nacionalista vasco por qué no les si usted me dice que ya es hora de que se les devuelva por qué no lo devuelven usted en este presupuesto

y ustedes por qué se niegan a devolverlo

sabe lo que le ocurre que ya no tienen la excusa ya no tienen la excusa es que el gobierno de españa nos obliga entonces esa excusa se ha acabado y cuando se acaba la excusa es que nos obligan hacerlo y usted puede cambiar pues seguimos sin hacer

no y claro las aportaciones a los fondos de pensiones de los funcionarios es que el gobierno de españa nos prohíbe hacerlo nos prohíbe hacerlo hay que hacer una enmienda a los presupuesto del gobierno de españa para quitarlo oiga

y dónde está en este presupuesto esas aportaciones en ningún sitio en ningún sitio en ningún sitio

aquí lo que hay es un paripé del partido nacionalista vasco alucinante

los recortes que hacen ellos de motu propio cuando ya no tienen la excusa de que nos obligan pues se viene aquí se hace un discurso de aliño verdad y quedamos muy bien me dice usted porque somos la comunidad autónoma

lo que le he dicho es que gastamos la mitad que hace cuatro años digo para recordárselo yo no le he dicho si gastamos más la mitad no me comparo con otros

con nosotros y le digo estamos invirtiendo la mitad que hace cuatro años

vale eso es lo que estoy diciendo y me dice y dónde está el empleo porque se hace usted la pregunta que yo le hago

dónde está el empleo y usted me dice el lehendakari cada vez que habla habla del empleo ya no si eso ya lo sé si en todas sus declaraciones es una de lasprioridades

porque le repito que de los trescientos casi trescientos millónes de euros casi trescientos millónes de euros pues a estas partidas

no me parezca bien que se le suba a los funcionarios el uno por ciento no yo no he dicho eso lo que digo

y el pago de los funcionarios no queda no queda nada eso es lo que le digo y si no queda nada pues no queda nada y usted me dice que los datos confirman que algo está cambiando oiga algo no mucho está cambiando mucho

pero no por lo que ha hecho este gobierno por lo que ha hecho el gobierno del partido popular en madrid con los votos en contra siempre del partido nacionalista vasco claro que está cambiando y mucho está cambiando todo podemos hablar de lo que usted quiera de la prima de riesgo del empleo de todo podemos hablar claro que está cambiando el cambio en este país

cuatro años hace cuatro años y nosotros lo que le llevamos cuatro años echando en cara a este gobierno es que no colabora en nada es que podíamos ir mucho mejor

y es lo que venimos planteando aquí desde hace cuatro años que nos pongamos en la vanguardia del crecimiento y de la creación de empleo

yo no sé por qué qué le pasa a usted con las calefacciones en las escuelas me sorprende

que piensa anunciarnos el gobierno próximamente porque yo cuando hablo de gasto corriente es evidente que no estoy hablando de esas cosas y usted lo sabe ahora si usted me lo saca así

a algún parlamentario que se pueden recortar el gasto en calefacción en las escuelas

yo espero que no se les ocurra llevarla a cabo pero vamos nuestras enmiendas ya sabe usted que no van por ahí me dice usted la única inversión del gobierno de españa es la y mire no es cierto pero sí le voy a decir una cosa la y tenía que haber estado abierta e inaugurada hace tiempo como usted dice usted se olvida

con un lehendakari que se llamaba ibarretxe que tenía un tripartito que tenía pactado

y la paralizaron ustedes cuatro años cuatro años y luego hubo otro gobierno en españa con el señor rodríguez zapatero con los apoyos suyos

en todos los presupuestos y la inversión fue la mitad de la mitad de la mitad que la del gobierno del partido popular en esta legislatura con sus votos

ustedes son responsables directos de esos retrasos durante todos esos años

ustedes y el partido socialista nosotros hemos llegado hace cuatro años

y mire me dice usted que cómo digo yo que tenemos los impuestos más altos que en madrid oiga lo digo yo y se lo dice

bastante clara y evidente verdad y da algún dato yo no se lo voy a dar tiene el copyright

eso parece que está claro tenemos el impuesto de sociedades más alto

mire yo cuando le he hablado de esto que tienen ustedes aquí como yo sí me creo la sensibilidad social del partido socialista

de los que tantos días y sesiones hablamos en este parlamento

en estos presupuestos para nada es evidente que el pacto responde a otro motivo damborenea jauna

pacto un acuerdo pnv partido socialista para que unos voten aquí y otros voten allí

que es en el congreso de los diputados pero ya nos encargaremos algunos
de que ese pacto no se pueda cumplir nada más y muchas gracias eskerrik asko erantzuteko

no se preocupe señor damborenea porque le he puesto unos ejemplos para que usted vea clarísimamente el gasto corriente del gobierno vasco se emplea perfectamente porque parece que escucha parece que usted tiene ánimo

unos ejemplos claros por los que se pudiera visualizar perfectamente sí me gustaría en el primer turno no

con un tema en concreto con lanbide y me parece que es muy importante muy importante valorar el trabajo que desde lanbide se está haciendo porque usted tiene información al respecto completa información al respeto que el gobierno vasco remite puntualmente al parlamento y sabe que vienen a ser unas cuatrocientos mil personas las personas

para que podamos despreciar el trabajo que desde allí se está haciendo y que además pueden pertenecer a más de uno de los colectivos que son atendidos en lanbide es importante decir también en la línea de lo que usted apuntaba ofrecerle unos datos

ciento once millónes de euros en formación ciento once millónes de euros en formación

en programas y servicios para la inclusión laboral entre ellos incluidos la orientación y la intermediación no he podido responderle en el primer turno

y lamentando no haberlo hecho que tenía que haberlo hecho en el primero

me parece interesante aportarle esta información

que es el veinte coma noventa le puedo decir todas me parecía que era un ejemplo de cuál es el nivel de endeudamiento de las comunidades y cuál es el nivel de endeudamiento nuestro del gobierno vasco de la comunidad autónoma de euskadi me parece muy importante cuando uno está ofreciendo datos dar del entorno que le circunda para saber efectivamente en ese contexto cómo está situado creo que eran unos datos que le podían aportar información

está usted y ha hecho alusión a la aprobación por parte del partido nacionalista vasco de los presupuestos

muy bien que usted la conoce muy bien y qué trajimos a euskadi el concierto económico el blindaje coincide con esto siempre velando por el bien de euskadi muchas veces solos y solas por qué no pagan la paga extra y usted dice

porque ahora nada les obliga a ello ya no vale poner excusas no sé cuál ha sido la palabra exacta que ha utilizado pero bueno el artículo ciento treinta y tres de la constitución se lo recuerdo le parece bromita le recuerdo la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

que han aprobado para que se pueda permitir el pago del segundo veinticinco por ciento de la paga y le recuerdo cuál es la última disposición de ese real decreto legislativo pues como lo dijimos bien claro en el debate que tuvimos en relación con este tema con la señora llanos

dice clarísimamente deberá estar suficientemente motivada

económica y financiera y desde luego nosotros entonces dijimos y ahora décimos que el compromiso del partido nacionalista vasco en el gobierno vasco

la paga extra del dos mil doce es clara y se pagará siempre sin poner en riesgo la sostenibilidad

porque ustedes nos obligan además a ello ustedes nos obligan además a ello

primero más quinientos más i dice usted yo no he dicho decía usted que en euskadi

que de ese incremento presupuestario trece coma siete millónes de euros

sí mire bien en la sección noventa y nueve trece coma siete millónes de euros a innovación un esfuerzo enorme y cincuenta y uno millónes será lo que eso es lo que a usted se le ha olvidado decir

impuestos más altos en cuanto a que disponemos de menos dinero creo que ya le ha quedado claro que eso

que no tiene un pase que aquí la disposición de dinero y que la sociedad vasca tiene un nivel de bienestar social en distintos ámbitos

importante gracias a eso de que disponemos de ese dinero y ese dinero se invierte bien pero es que le diré que por ejemplo en el impuesto de sociedades

son ligeramente más favorables porque independientemente de los tipos nosotros tenemos mejores deducciones en cuestiones que para nosotros son muy importantes

nuestras deducciones son mejores son mejores las deducciones medioambientales nuestra

tenemos una reserva de inversiones que en el estado no tienen admitimos la deducibilidad de los deterioros

todas las deducciones siguen siendo más beneficiosas en el país vasco sí

que todos sabemos en el desarrollo de la ley de dependencia y por la vía de gasto cuánto invertimos nosotros en esa materia esa es la realidad y hay que tener en cuenta el conjunto

del partido popular la alternativa del partido popular ha dicho usted sabe cuál es la alternativa del partido popular

la alternativa del presupuesto en papel mojado la de papel mojado porque el presupuesto que ustedes en madrid han aprobado no vale para nada no vale para nada porque les dejan les dejan desde europa les alertan les dicen bueno bien hala hala para adelante con ese presupuesto el gobierno que venga que lo cambie que recorte ocho mil millónes mínimo de recortes van a tener que hacer el gobierno siguiente

hacer un presupuesto que no sirve para nada que no es ninguna referencia el partido popular sabe qué es lo que ha hecho

para durante seis meses ahora en vísperas de una campaña electoral echar la casa por la ventana echar la casa por la ventana

con un ejercicio de irresponsabilidad política enorme y dejando el marrón al siguiente dejando el marrón al siguiente y veremos porque veremos porque el tiempo pasa y uno suele ser testigo de las cosas que van pasando

a que en marzo hagamos una valoración de toda esta política irresponsable